maneiro jauna zurea da hitza gracias presidenta yo lo que voy a pedir es la posposición de la votación referida a este punto

a la compatibilidad o no del parlamentario de eh bildu

denuncia presentada el día diecinueve de septiembre ante la fiscalía

en relación a la posible inhabilitación del señor iker casanova para ostentar empleo o cargo público que a día de hoy quizás pueda que siga vigente

para averiguar si el señor iker casanova ha cumplido la pena de inhabilitación que le impuso en sentencia firme el tribunal supremo por pertenencia a eta

están ahora mismo en manos de la fiscalía del tribunal superior de justicia del país vasco después de que se las haya remitido la audiencia nacional es probable por tanto que el parlamentario de eh bildu presunto

habiendo cumplido la pena de cárcel no haya cumplido la pena de inhabilitación

esta posibilidad se está investigando por parte de la fiscalía del tribunal superior de justicia del país vasco es por esto por lo que pedimos que se posponga la votación de este punto más allá de que a nosotros nos parezca una absoluta vergüenza que un parlamentario con semejante trayectoria o una persona con semejante trayectoria pueda ser parlamentario vasco

más allá de esto pensamos que hay razones jurídicas para

votar en contra de lo que se propone aquí ya digo que la fiscalía está investigando y por lo tanto yo creo que lo razonable es esperar a que diga

esta posición del grupo upyd la apoyan los demás grupos pero desde luego es la nuestra

vamos a sí señora presidenta nosotros también solicitaríamos la posposición de este punto habida cuenta de las dudas que existen sobre

usted no está aquí para que haga posicionamiento político o defienda a una de las partes

independientemente de lo que se dijera en esa comisión estamos

insistimos la fiscalía está investigando este hecho puesto que la fiscalía está investigando este hecho me parece un tema lo suficientemente

las personas que estáis implicadas en el tema benga bozkatu dezakegu

solo digamos que para recordar que no estamos de acuerdo con el modo en que se eligen a los miembros del consejo de administración de e i te be y queremos recordarlo

en el debate de hoy decía el señor fidalgo ex secretario general de comisiones obreras que el mayor proceso de privatización que existe a día de hoy en españa es la ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de la sociedad esta afirmación del señor fidalgo resume perfectamente la opinión de upyd en relación a la forma de elegir a los miembros del consejo de administración

es decir nosotros nos posicionamos en contra de que los miembros del consejo de administración de e i te be sean elegidos por los partidos políticos o por los grupos parlamentarios

pensamos que debe hacerse de otra manera y por lo tanto no vamos a participar en la votación de hoy no estamos de acuerdo con que sean los grupos parlamentarios

de e i te be nosotros somos coherentes allí donde hemos tenido la oportunidad de formar parte de un consejo de administración de una televisión pública

ya nos negamos a presentar incluso candidatura para formar parte del consejo de administración de e i te be por lo que les digo porque pensamos que no tienen que ser los partidos políticos

la elección del consejo de administración debe hacerse de otro modo nosotros hemos renunciado a estar presentes en órganos semejantes en todos los lugares donde tenemos representación ya lo hicimos en radio televisión española y ya lo hicimos en telemadrid

euskadi y lo que necesita e i te be es un consejo de administración que defienda la pluralidad la profesionalidad la independencia la neutralidad la objetividad

en absoluto creemos que es mala idea tratar de llevar al consejo de administración de e i te be

entre los distintos partidos políticos ya existe al fin y al cabo la comisión de control de e i te be y ya existe este parlamento para que los grupos parlamentarios podamos realizar de control del ente público nosotros por lo tanto apoyamos otro sistema de elección de los miembros del consejo de administración de e i te be

en función de sus méritos profesionales y su capacidad a través de una convocatoria pública a la que cualquier persona pudiera presentarse digamos que esta es

intenta colocar a sus amigos en ese consejo de administración pensamos que es un grave error debería hacerse una convocatoria pública para que fueran elegidos los mejores tanto para ser director general como para ser miembro del consejo de administración por todo

para no dificultar la votación que se pretende sea por unanimidad lo que finalmente creo que debo hacer es salir del pleno

todos ustedes voten a favor de que se mantenga todo esto tal como está yo en todo caso hago un llamamiento expreso a todos los grupos parlamentarios para que saquen sus manos del consejo de administración de e i te be en fin esa es nuestra posición

compartimos desde luego la preocupación por lo que ocurre

en israel en palestina de alguna manera señora ubera

está un poco superada por determinados acontecimientos desde luego que eran una realidad en el momento de la firma de la iniciativa el mismo día que usted firmaba esta iniciativa era el diecisiete de julio pues el parlamento europeo avanzaba aprobaba una resolución sobre la escalada de la violencia entre israel y palestina

llamamientos políticos con declaraciones sobre continuar con las negociaciones hacia la conformación de los dos estados y también se preocupaba esa resolución del parlamento europeo sobre

con posterioridad a esa resolución se produjo

y sobre la situación humanitaria también en el marco de naciones unidas es donde se está tratando

de avanzar poniendo el acento en israel o en palestina para lo bueno

en cualquier caso hemos oído recientes declaraciones en el consejo de seguridad en el entorno de las naciones unidas en relación con cómo seguir avanzando el

lo es nosotros décimos era importante en el marco de las conclusiones del consejo europeo de treinta de agosto sobre

de alto el fuego alcanzado bajo los hospicios de las autoridades egipcias ya se instaba también a las partes a respetarlo plenamente a proseguir con las negociaciones para conseguir una mejora sustancial

la franja de gaza y decía el consejo europeo en merced al levantamiento del régimen de bloqueo en dicha zona así como que se ponga fin a la amenaza que representan hamás y otros grupos militares activos

debe apoyarse en la supervisión y verificación internacionales para garantizar la plena aplicación de un acuerdo general se decía que todos

de gaza incluidos los ámbitos de seguridad y la administración civil el consejo europeo manifestaba su preocupación por la situación y decía desastrosa situación humanitaria en la franja de gaza y exhortaba a que se permita

tenía consecuencias también reiteraba esa disposición de la unión europea a contribuir a una solución global sostenible nosotros ahí se va a enmarcar en la posición de la unión europea del consejo europeo del parlamento europeo y de sus resoluciones y declaraciones y hablaba

y decía que la franja de gaza formará parte de un futuro estado de palestina eso lo decía el consejo europeo de treinta de agosto y nosotros desde luego estamos

una enmienda de transacción juntamente con el grupo nacionalista y

la cuestión y además es una declaración con contundencia y con contenido en relación con las cuestiones generales del conflicto

como usted requería la enmienda de transacción vuelve a manifestar la condena por las flagrantes violaciones de los derechos humanos y de los principios de derecho internacional perpetrados

y nos solidarizamos con las víctimas muy especialmente con el pueblo palestino objeto de lo que se califica como una masacre

eso ahí consta y eso lo hemos reconocido y eso se ha dicho también en los ámbitos

recogemos en la enmienda de transacción las conclusiones del consejo europeo de treinta de agosto de dos mil catorce a las que me he referido hace un momento desde luego que

en la reconstrucción de la franja de gaza y en la consecución de un escenario de paz que

hoja de ruta en relación con este tema que se proteja la seguridad de la población tanto la palestina como la israelí y establezca una solución a largo plazo a una situación

también en algún momento declaran que para la resolución definitiva del conflicto entre israel y palestina es necesaria la creación de dos estados que convivan en paz y seguridad

y con el trabajo de negociación que hay auspiciar y determinar y finalmente y en línea con lo que a usted le preocupa y efectivamente a todos

la franja de gaza e insta a la agencia vasca de cooperación al desarrollo a aplicar los recursos que tenga a su disposición para prestar de manera eficaz asistencia humana y material a la población palestina está bien claro que tenemos un instrumento

la ayuda humanitaria es una agencia vasca de cooperación

pero es la agencia vasca de cooperación quien canalizará a través de las organizaciones no gubernamentales y conocemos a muchas en el ámbito sanitario que trabajan

ahí tiene que estar la ayuda y ahí tiene que estar el esfuerzo y por eso mismo

dónde tenemos que poner el acento a la hora de que sea

canalice quien coordine los esfuerzos en relación con la ayuda humanitaria humana material a la población palestina yo creo que en ese sentido nuestra enmienda de transacción es clara

vemos también que en línea con lo que decía antes de que la posición de mi grupo va a estar enmarcada en lo que son las resoluciones y los argumentos de la unión europea de los veintiocho y de naciones unidas pues ya las últimas declaraciones son que la unión europea expondrá a próximamente en un documento sobre el que se ha informado la línea roja sobre la ocupación

y jerusalén este con el fin de preservar una solución que se va a avanzar yo creo que efectivamente ya la unión europea también considera que la preservación de la solución de los dos estados es una prioridad y ya empieza a hablar de líneas rojas

el embajador de la unión europea va a actuar en los próximos

se pueda seguir avanzando por el camino que nosotros reclamamos en la enmienda de transacción muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

sí gracias presidenta claro cuando uno

delante una iniciativa de estas características siempre se pregunta qué es lo que nosotros podríamos decir y hacer

desde un parlamento digamos con escasa relevancia

vasco qué es exactamente lo que nosotros podríamos decir y hacer allí y en ocasiones incluso nos preguntamos si merece la pena que

lejos no tanto porque no sean importantes sino porque nosotros no tenemos competencias en la materia y efectivamente después de pensarlo dijimos que es un asunto importante no sabemos la incidencia que tendrá lo que diga este parlamento seguramente ninguna pero puesto que se ha producido

llevada a cabo por israel y como consecuencia de eso ha habido centenares de víctimas inocentes al menos podemos decir algunas cosas en relación a esta cuestión y es lo que nosotros hemos intentando

enmienda de totalidad nosotros pensamos que lo mínimo que podríamos hacer era condenar condenar la incursión militar israelí es evidente que se debe obligar

a que cese los ataques terroristas contra israel desde gaza y todo esto evidentemente es profundamente criticable pero ese objetivo no puede justificar

y sistemático bombardeo con

entre una población acorralada y tomada como rehén y ante esta injusticia creo que

con esa actuación concreta del ejercito de israel y con otras actuaciones que se han llevado a cabo y que han provocado masacres similares con centenares de víctimas inocentes por lo tanto eso en primer lugar porque además creo que era lo que

venía a debatir y se venía a proponer por lo tanto condena absoluta ante esos hechos absolutamente injustificables podemos hablar desde luego

contra una población indefensa y acorralada por lo tanto nuestra más firme condena y por supuesto solidaridad ante las víctimas inocentes de esta masacre o de masacres semejantes que se han producido en esa zona del mundo durante

durante los últimos años de ahí nuestra enmienda que proponía lo siguiente exigir el cese inmediato y definitivo de la violencia entre israelíes y palestinos tanto la cruel e inaceptable operación militar israelí y la ocupación terrestre de la franja de gaza como el lanzamiento injustificado de misiles por parte de

y muestra su solidaridad con las víctimas inocentes que han sido asesinadas durante las últimas semanas

a las autoridades israelíes como a las palestinas a que se comprometan en el cese de la violencia y en el establecimiento de un firme compromiso que los lleve a la resolución de sus diferencias mediante el diálogo el respeto a los derechos humanos y los procedimientos democráticos

el pleno derecho del otro a existir como estado soberano el derecho internacional para resolver sus diferencias y todos los derechos humanos para la totalidad de los israelíes

en nuestra enmienda desde luego este es un asunto sobre el que las instituciones europeas y la unión europea deberían

en los últimos tiempos y en concreto lo que se ha venido haciendo en las últimas semanas o

la unión europea en sus instituciones estaban debatiendo

algo absolutamente vergonzoso en lugar de centrarse en resolver

tratar de convertirse en un agente internacional lo suficientemente importante como para que puedan tener incidencia sus decisiones lo cierto es que mientras todo esto ocurría en la unión europea había personas que estaban discutiendo sobre el reparto de cargos y

decirlo porque son las instituciones europeas especialmente y la unión europea ese organismo que tendría mucho que decir para resolver esta cuestión en fin nosotros lógicamente como también consideramos que la solución es la existencia la constitución de dos estados seguros donde se respeten los derechos humanos y donde pueda haber una convivencia lo más pacífica posible o plenamente pacífica más allá de las divergencias políticas

una transaccional con el grupo popular y el grupo nacionalistas vascos por qué

ha sido el grupo nacionalistas vascos quien antes nos ofreció esta posibilidad y únicamente a primera hora de la mañana de hoy el grupo socialista nos ha enviado su propuesta que leída rápidamente nos parece que está bien sinceramente creo que la transaccional nuestra está bien y creo que la transaccional que han firmado ustedes también está bien está perfectamente bien no tengo ningún problema

esa transaccional creemos que se recoge lo fundamental y esperamos que

ayudar a resolver un conflicto que dura ya décadas

para mostrar nuestro contundente rechazo a determinadas acciones criminales llevadas a cabo durante las últimas semanas gracias eskerrik asko maneiro jauna

que sobre la población civil palestina de la franja de gaza ha tenido el desencadenamiento de la operación muro protector el pasado ocho de julio después de otros acontecimientos violentos

el ejército de israel puso en marcha la operación a la que nos hemos referido y causó durante cincuenta días

se estima que aproximadamente el setenta por ciento de ellas eran civiles incluyendo casi quinientos menores

queremos mostrar nuestra solidaridad con los allegados de todas estas víctimas además el desproporcionado uso de la violencia por parte de israel aparte de esa masacre ha causado más de diez mil heridos con un porcentaje muy importante de menores

añadido a esto se han destruido un altísimo número de viviendas campos de cultivo y todo tipo de infraestructuras sanitarias energéticas de suministro de agua potable etcétera en la franja de gaza el primer objetivo que queremos conseguir con esta iniciativa es el que expresábamos al inicio impulsar la ayuda humanitaria haciendo hincapié en el área de salud

queremos que la comunidad internacional exija a israel que trabaje

reclamamos a la unión europea mayor energía y una acción diplomática efectiva que haga replantearse a israel el sistemático recurso a la violencia desproporcionada

para garantizar su seguridad en el caso de que el estado de israel

no solo las relaciones comerciales en el sentido que se expresó en la resolución del consejo europeo

sino incluso la suspensión del acuerdo de asociación de israel con la unión europea

tienen derecho a vivir en condiciones dignas y no las que les impone el bloqueo que ha superado ya

impiden un desarrollo económico mínimo que permita superar las altísimas cotas de desempleo que se sufren en la franja de gaza y que en consecuencia hacen

personas dependan de la ayuda humanitaria internacional para sobrevivir

para los palestinos y las detenciones arbitrarias son vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos y que por lo tanto deben desaparecer

internacional estamos convencidos que solo a partir de la coexistencia de los dos estados

los acuerdos que garanticen la paz y la seguridad para ambos el respeto a los derechos de sus ciudadanos

creemos en el ámbito de la unión europea debe trabajarse de manera coordinada al reconocimiento del estado palestino es el momento

como estado observador no miembro desde hace más de tres años tiene un status internacional y la inmensa mayoría de los países entienden

pasa por el reconocimiento mutuo de los dos estados como mejor solución para acabar con la violencia

estamos convencidos de que el mutuo reconocimiento entre israel y palestina es la mejor contribución al diálogo al restablecimiento de las negociaciones y en definitiva a la paz en oriente medio queremos por otra que el gobierno vasco se implique en la ayuda humanitaria pero también

y para en su caso se apliquen las sanciones económicas aprobadas por la unión europea lamentamos

entre todos los grupos porque pensamos que estos asuntos deberían ser más materia posiblemente de una declaración institucional que de un debate entre los diferentes grupos

en el énfasis que nosotros y el grupo eh bildu que hemos llegado a una transacción hacemos

a la crítica a israel a la exigencia a israel porque consideramos que las vulneraciones de los derechos el recurso sistemático a una violencia desproporcionada siempre viene desde ese punto desde el estado de israel el otro punto quizás también sería una mayor implicación

para en estos asuntos en la línea de lo que el consejo europeo de relaciones exteriores ya aprobó en dos mil doce que es instar a que no se hagan que dentro de los

no tengan vigencia en los territorios ocupados por asentamientos en cisjordania por ejemplo con lo que ya iríamos no solamente a hablar de la situación

insisto lamentamos no haber llegado a acuerdo posiblemente la falta de tiempo también ha sido un factor que ha condicionado esto por lo tanto desde nuestro grupo nos sumamos a lo que ya han dicho aquí otros portavoces y si a lo largo de esta sesión

y si la presidencia lo permite posponer la votación

para que en el transcurso del mismo podamos llegar a un acuerdo creemos que la situación de emergencia humanitaria en palestina merece que haya un acuerdo unánime

entrar en debate de cuestiones que nosotros consideramos importantes pero que como digo con un poco más de tiempo posiblemente hubiéramos logrado llegar a acuerdos y nada más muchas gracias

creo que hoy es complicado no sé anunciar próximos debates en relación con esta cuestión

hay alguna iniciativa sobre la mesa así que igual será el marco de futuras iniciativas en la que podamos hacer ese esfuerzo pero hoy la transacción es complicado

hay elementos básicos en estas cuestiones por los que nosotros no vamos a pasar

militar en lo que es una defensa desigual efectivamente lo hemos reconocido eso no es ser genocida eso no es ser genocida para nosotros israel no es un estado genocida

asustado ultradefensivo aislado con un entorno muy complicado

y por ello pues muchas veces agresivo en exceso

por otro lado solidaridad con el pueblo palestino sí y lo hemos dicho pero solidaridad también con el pueblo israelí el pueblo israelí está sometido

de los grupos terroristas que le atacan muchas veces eso lo conocemos el terrorismo del que es objeto el pueblo israelí pues también tendremos que ser solidarios con él tampoco viene nada de eso no estamos de acuerdo y después

palestina en algunos casos por parte de sus autoridades y por los grupos que le apoyan

y terrorista en muchas ocasiones las autoridades de los grupos que le apoyan en relación con el uso de cohetes de

que decirlo no se dice nada yo decía antes

que se puede hacer más desde luego pero ya se están dando pasos lo hemos dicho antes

también en lo que son las últimas informaciones en relación con las líneas rojas que

con cuestiones importantes en concreto las últimas informaciones son que la unión considera que es la preservación de la solución de los dos estados una prioridad y dice que después de una ronda de

al sur de jerusalén y de la intención de seguir construyendo en la colina

de la misma ciudad durante las conversaciones internas los veintiocho han decidido trasmitir un mensaje claro sobre la postura

ahí están las claves desde luego en ese sentido yo pediría a la presidenta que una vez finalizado este punto votásemos y ahí está la solución democrática

a esta cuestión en relación a la posición de eh bildu y yo quiero mostrar mi indignación ante el hecho de que eh bildu condene las vulneraciones de derechos humanos producidas allí

y se niegue a condenar las vulneraciones de derechos humanos llevadas a cabo y perpetradas aquí y esto evidentemente hay que decirlo cuando se trata de un asunto como este y que encima

a parte al menos de los grupos parlamentarios de esta cámara en relación a la condena de determinadas vulneraciones de derechos humanos esto a mi personalmente me produce una gran

señora ubera quiero mostrar mi indignación ante el hecho de que eh bildu condene las actuaciones de israel y sin embargo siga sin condenar

las acciones terroristas de eta llevadas a cabo aquí contra conciudadanos nuestros y esto es ciertamente vergonzoso

ante algunos hechos que nosotros también hemos condenado y condenamos y tanto silencio tanta complicidad y tanto ante las acciones criminales de eta perpetradas aquí es imposible por lo tanto transaccionar nada con eh bildu especialmente cuando se habla de determinadas cuestiones como las que se debate en el punto de hoy por lo tanto nuestra hablaba usted de coherencia señora ubera ustedes condenan las acciones criminales de allí que nosotros condenamos igualmente

cómplice en relación a las acciones criminales perpetradas aquí por un grupo terrorista contra conciudadanos nuestros esto algo habrá que decir nosotros en todo caso preferimos votar la transaccional que hemos firmado con el grupo popular
y con el grupo nacionalista vasco nada más eskerrik asko

estamos vamos hacia atrás yo antes he hecho una propuesta en base precisamente al guante que nos había lanzado el señor maneiro diciendo que vamos a ver si tratamos a lo largo de este pleno de llegar a un acuerdo

de los dos grupos que firman con usted han negado esa posibilidad de llegar a acuerdo usted se va atrás yo creo que

o esa inflexibilidad que usted ha mostrado aquí en su última intervención

por eso nos hemos nosotros sumado a algo que consideramos que es oportuno en estos momentos como es el llegar a acuerdo entre todos con un asunto

de ayuda humanitaria que se trata de ayudar a una gente que lo está pasando muy mal que se trata de ayudar a quienes peor lo están pasando que se trata

que lleva muchísimos años desde mediados del siglo pasado

en vez de acercar posturas lo que hacen aprovechando otras circunstancias

también la intervención del señor barrio nos ha llevado a un punto que en el primer turno no se había tratado y es el equiparar las dos violencias en este país estamos hablando de que no se pueden equiparar violencias que no se pueden equiparar víctimas eso es lo que nosotros pretendíamos y eso es lo que nosotros queríamos hacer al respecto

no consideramos que todos que se pueden equiparar las violencias vamos a ver el estado de israel es el que viola los acuerdos internacionales

en los territorios ocupados es el que mantiene el bloqueo económico

el estado de israel impone asentamientos de colonos en territorios bajo jurisdicción

esto no es unos brotes de violencia puntuales esto es violencia sistemática y constante y por eso nosotros en la primera

lo hemos querido reflejar de esa manera en nuestra enmienda transaccional queremos hacer hincapié en eso queremos hacer una crítica expresa al gobierno de israel porque consideramos que es

en oriente próximo que tiene en su mano solucionar el conflicto que tiene en su mano hacer que

en ese territorio por eso nosotros hacemos énfasis hacemos énfasis en esa crítica y en las exigencias al gobierno de israel por supuesto que denunciamos la violación de todos los derechos humanos y también las acciones terroristas que pueda haber por parte

de grupos palestinos pero consideramos que equiparar una violencia y otra no es correcto en estos momentos porque hay insisto quien

decisiones internacionales acuerdos internacionales y quienes están sufriendo las consecuencias que es fundamentalmente la población

esto es lo que a nosotros nos llevaba a solicitar de los grupos de esta cámara un mayor acuerdo es cierto quizá no hemos tenido y lo he dicho en mi primera intervención el tiempo suficiente

creo que merece la pena y no enfrascarse en cuestiones que no ocupan este debate y que sea la justificación

pongamos como argumento justificativo otras cuestiones para no llegar a acuerdos sobre algo que desde nuestro punto de vista tiene un superior como es la ayuda humanitaria insisto ya solo queda la portavoz del grupo parlamentario nacionalistas vascos pero sigo manteniendo

para tratar de consensuar algo que es de justicia pero de justicia con

en discusiones que no tienen que ver con esto sino que lo que tratemos de lograr

sea una declaración de este parlamento una declaración unánime para lo que pretende esta iniciativa que es

y ayudar a la población civil palestina que es la que sufre lasconsecuencias del conflicto muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna amaitzeko

baina azkeneko esaldiak diola hau objeto de una masacre por la desproporcionada actuación militar por parte del estado de israel

yo creo que hablamos del reconocimiento de todas las víctimas y lo que hablamos en este país también puede ser de aplicación para los otros

y todo eso sin negar que evidentemente estamos hablando de una masacre por el uso de una fuerza desproporcionada de una actuación militar que tiene

si nos fijamos con atención en la evolución presupuestaria de las ayudas de emergencia social podríamos obtener varios datos significativos y vamos a poner algunos ejemplos

es decir un once por ciento y aún así las solicitudes que recibieron los ayuntamientos supusieron un veintiséis por ciento más del presupuesto con el que contaban

en uno coma cinco millónes de euros es decir un siete por ciento pero los ayuntamientos estiman que serán necesarios unos diez millónes de euros más

del presupuesto como verán el desequilibrio entre lo que presupuesta el gobierno vasco y la necesidad real es notorio además conviene resaltar que no hay duda de que los conceptos a los que se destinan las ayudas de emergencia social han ido cambiando

y actualmente la mayoría de las necesidades que se cubren se corresponden a la vivienda para gastos de alquiler

y en un segundo término para luz o calefacción son gastos hoy en día sumamente importantes para las unidades convivenciales porque hay personas que se ven en la tesitura mes a mes de tener que elegir entre pagar la factura de la luz

o pagar la calefacción por poner algunos ejemplos necesidades básicas a las que ninguna persona tendría que renunciar beste aldetik

parlamentarios generalmente son mandatos que el grupo político que lo sustenta ha apoyado pero en otras ocasiones desoye a toda la oposición y este es el caso que hoy nos ocupa la proposición no de ley que euskal herria bildu ha presentado contiene punto por punto

en octubre del año pasado una enmienda apoyada por todos los grupos de esta cámara excepto por el grupo nacionalista y ustedes han pasado por alto

no interesa como creemos que es un buen acuerdo lo hemos presentado pero parece que todavía hoy en día algunos grupos algunas personas no admiten públicamente que euskal herria bildu presenta propuestas buenas entonces temíamos que esta propuesta no saliese por tanto

una enmienda transaccional en la cual se recogen esos tres primeros puntos que acordamos en octubre es decir instamos al gobierno a ampliar la dotación presupuestaria para financiar las ayudas de emergencia social

las que reciban los ayuntamientos durante el año dos mil catorce instamos a que de máxima prioridad a la tramitación

para cubrir cada uno de estos gastos específicos siempre y cuando se cumplan los requisitos instamos al gobierno vasco a que en el proyecto de presupuestos del dos mil quince

y por otra parte el cuarto y último punto es el que el partido socialista el grupo socialista incorporaba en su enmienda de transacción

a pesar teniendo en cuenta el incremento la demanda de las aes se modifique

esto de manera coyuntural ese es el acuerdo no hay más tres primeros puntos los mismos que en octubre del año pasado y uno más incorporado por el grupo socialista hau da

sí gracias asunto sin duda importante sobre el que tratamos permanentemente en este parlamento y que suele finalizar con

parecido la oposición en bloque exige al gobierno básicamente dos cosas por un lado que aumente la dotación presupuestaria para financiar las ayudas de emergencia social

para garantizar la satisfacción de todas las solicitudes que obviamente cumplan los requisitos legales y que en el proyecto de presupuestos del año siguiente

al próximo presupuesto que sería el del año dos mil quince y esto es básicamente lo que viene a decir

planteada por upyd y esto es lo que venimos defendiendo durante los últimos meses y durante los últimos años estas dos cuestiones que nosotros consideramos absolutamente fundamentales y también se suele repetir algo en este parlamento y es que

incumple el mandato parlamentario de esta cámara niega que sea posible

no hay disponibilidad presupuestaria suficiente se nos repite y solamente en algún caso decide incrementar presupuestaria pero siempre de manera insuficiente y por debajo de lo que los grupos de la oposición le piden lo cierto es que para dos mil catorce se presupuestó una cuantía superior a la de dos mil trece veinte millónes

euros una cuantía que sin embargo sigue siendo insuficiente aunque las cuantías por lo tanto

y de beneficiarios de este tipo de ayudas también han aumentado de modo exponencial debido a la crisis y han aumentado porque las políticas

con esas situaciones de necesidad es decir si las políticas impulsadas

otras evidentemente habría menos ciudadanos necesitados de este tipo de ayudas ya debatimos esto en octubre de dos mil trece incluso también en junio de dos mil catorce y en otras ocasiones anteriores

reitero que en opinión de upyd si hay dinero suficiente para cubrir todas las ayudas necesarias porque evidentemente es cuestión de priorizar en esto se basa o se debería basar la actuación de cualquier gobierno de priorizar y lo cierto es que a día de hoy sigue habiendo partidas millónarias que se dedican y destinan a la euskaldunización

al deporte profesional hay partidas que se dedican a la financiación de determinadas obras como puede ser el campo de futbol de anoeta

dedican al campo de futbol de san mames barria y además todas esas reformas que habitualmente reclama upyd siguen sin hacerse desde la reforma del entramado institucional

del sector público societario la reducción de la grasa de la administración o la permanente y la mejora de la lucha contra el fraude fiscal además de otras

destinada a e i te be nosotros pensamos que el gobierno debe priorizar y para nosotros este gasto en absolutamente prioritario de ahí

enmienda y por parte de upyd mientras nos se tomen determinadas medidas y no se impulsen determinadas reformas seguiremos recordando que hay que destinar los recursos públicos a lo verdaderamente importante es cuestión por lo tanto de prioridades guk ez dugu onartuko murrizketa sozialik erreforma batzuk ez diren bitartean eta lehentasunak ondo erabakita ez dauden bitartean no vamos a aceptar ningún tipo de recorte social ni ninguna medida

y esta posición es además coherente con nuestra labor como partido de la oposición y también con el progresismo de un partido político para el cual

lo están pasando es algo absolutamente prioritario y vamos a seguir defendiendo esta posición de manera

el gasto social es indispensable y no vamos a admitir ningún tipo de recorte por lo tanto por parte del gobierno se dice que no hay dinero pero es una excusa

es hacer todo lo posible para que efectivamente pueda haber

administrador del dinero público deberá tomar determinadas decisiones e impulsar determinadas reformas que son las que nosotros le exigimos para que puedan cubrirse estas necesidades y se atienda por lo tanto de mejor manera a los ciudadanos

en nuestra enmienda de totalidad esto es lo que siempre hemos defendido y esto es lo que todos los grupos de la oposición van a volver a exigir hoy al gobierno vasco

debatimos en esta cámara el asunto de la financiación de las ayudas de emergencia social

de estas ayudas no es la primera vez pero esperemos que pueda ser la última aunque no sé si albergamos muchas esperanzas después de

incumplimientos de los acuerdos parlamentarios de este gobierno en relación a esta cuestión concreta el último pronunciamiento

se produjo el pasado diez de octubre de dos mil trece a propósito del debate conjunto de tres iniciativas de los grupos partido socialista de euskadi eh bildu y partido popular

el grupo que sustenta este gobierno y le decíamos

las cosas que le repetimos hoy en este debate primero que ampliara la partida inicialmente prevista que luego se tuvo que ampliar en dos millónes de euros esa partida inicialmente

que como digo resultó insuficiente y también le pedíamos que en los siguientes presupuestos

sí se incrementó la partida pero en un siete por ciento también y como se ha dicho ahí llegando

de presupuesto inicial nosotros como ya vaticinamos que no iba a ser suficiente esa cantidad sí que tengo también que recordar que presentamos una enmienda

y nos quedamos prácticamente solos porque desde luego el partido que apoya al gobierno votó que no pero también fue sorpresa que el partido socialista que defiende estas

millónes más y como vemos pues estamos como estamos

ordaintzeko estas prestaciones las ayudas de emergencia social estas ayudas están reguladas en la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social son prestaciones periódicos de naturaleza económica subvencional para hacer frente a gastos específicos de carácter ordinario extraordinario para prevenir evitar y paliar situaciones de emergencia social

para el que han sido concedidas estas ayudas son gestionadas por los ayuntamientos pero la financiación corresponde

el habilitar las cantidades o el consignar mejor dicho las cantidades necesarias para cubrir la demanda existente corresponde al gobierno vasco en sus presupuestos y en una partida económica concreta a tal fin por lo tanto si el gobierno no las dota de forma económica suficiente son los ayuntamientos los que luego se ven obligados a completar

disponibilidades presupuestarias se lo permiten o también en la medida de la voluntad política son muchos ayuntamientos los que deciden completar esas cantidades hasta llegar a la totalidad de las solicitudes hay otros ayuntamientos que también deciden

las cuantías entre esos ayuntamientos tengo que destacar que está el ayuntamiento de vitoria

alcalde además está en esta cámara como parlamentario y que ya el año pasado cuando debatimos esta cuestión yo misma señalaba

que el ayuntamiento de vitoria iba a tener previsiblemente como así fue

en las aes y por lo tanto iba a tener que poner una cantidad adicional como también le está pasando este año que

porque no le llega con la cantidad inicialmente prevista por parte del gobierno vasco y me refería a la minoración de las cuantías porque precisamente el ayuntamiento de vitoria y su alcalde

y por lo tanto satisface todas las solicitudes otros los hacen señora aburto pero no el alcalde de vitoria porque considera que estas ayudas tienen que ir destinadas a aquellas personas que realmente lo necesitan y por lo tanto si hay solicitudes hay que cubrirlas hay que pagarlas y el que debería de pagarlas es el gobierno vasco pero mientras el gobierno vasco no lo hace pues la voluntad de

está el satisfacer las solicitudes que se cursan en sus ventanillas como decía el partido popular viendo la previsión de lo que está pasando todos los años viendo el escenario de crisis económica viendo también que se modificaron los límites patrimoniales presentamos esa enmienda a los presupuestos de incrementar la partida inicial

no salió nuestra enmienda el partido que apoya al gobierno y el partido socialista votaron que no y por lo tanto no pudo salir adelante

dos mil ocho se señalaba que los presupuestos de la comunidad autónoma del país vasco tenían que cubrir de manera suficiente todas las demandas de las ayudas de emergencia social

de forma expresa que se consignarán en los presupuestos generales de la comunidad autónoma del país vasco los recursos económicos suficientes

esta ley que aprobamos en diciembre del dos mil ocho estableció que los presupuestos de la comunidad autónoma tenían que cubrir de manera suficiente

y además estableció una novedad que era que no hubiera límite presupuestario para ello el gobierno debía destinar todo el dinero que fuera necesario y la mayor novedad era que no había límites presupuestarios

en consecuencia es la propia ley y no nuestra postura la que establece que no hay límites que no pueda

que en el anterior gobierno del partido socialista presentó una iniciativa para que se garantizara la suficiencia financiera de las ayudas de emergencia social

es porqué el partido nacionalista vasco ha cambiado de posición y lo que decía en ese momento que posibilitó también que se aprobara un acuerdo por unanimidad pues no

y ahora están en el gobierno y en este caso con toda

muy concreta que por lo menos la del partido popular es la de siempre que las ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan y que en el sistema estén los que tienen que estar

que les da el gobierno vasco el que el gobierno vasco habilita para cubrir las ayudas de emergencia social y puesto que tiene la competencia para ello pues debe hacer frente a la financiación correspondiente

se ha llegado a una enmienda de transacción nosotros presentamos una enmienda en la que reproducíamos íntegramente también el acuerdo al que se llegó el pasado diez de octubre y por lo tanto apoyaremos dicha enmienda de transacción sí tengo que decir que tenemos una pequeña discrepancia en el último

pero yo creo que es una cuestión de matiz porque cuando se señala que

incorporando un artículo a fin de garantizar la cobertura suficiente nosotros entendemos que la ley y tal y como ha señalado y que además lo explicaba muy bien la señora mendoza cuando

del partido nacionalista vasco decía que era suficiente obviamente y que el artículo noventa y uno y la disposición adicional de la citada ley lo decía muy claro por lo tanto volvemos a reiterarnos en nuestra

de volver a solicitar al gobierno vasco que amplíe la dotación presupuestaria prevista para este año porque a los ayuntamientos obviamente no les va a llegar con la cantidad inicialmente consignada que se dé máxima prioridad a la tramitación de las oportunas transferencias y que también en los próximos presupuestos se consigne la partida correspondiente a la cantidad suficiente

y una vez más en este asunto vemos que la voluntad de este gobierno es no satisfacer la totalidad de la demanda de las ayudas de emergencias social besterik gabe eskerrik asko

consejero efectivamente el diez de octubre de dos mil trece debatíamos en esta cámara

e instábamos al gobierno vasco ampliar la dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas de emergencia social y a consignar en los presupuestos del dos mil catorce la partida económica suficiente para atender las solicitudes de aes que cumplieran con los requisitos establecidos para tal fin fruto de aquel acuerdo el gobierno amplió

a finales del dos mil trece y consignó veinte coma cinco millónes de euros en los presupuestos del dos mil catorce sin embargo

porque la consignación prevista no ha sido suficiente y porque la demanda de las aes se ha disparado es bueno recordar

en marcha del plan de lucha contra la pobreza en la comunidad autónoma del país vasco hace veinticinco años las ayudas de emergencia social han constituido un pilar importante en la lucha contra la pobreza y la exclusión social

a las necesidades perentorias y urgentes que están surgiendo en situaciones de carencia o estrechez de recursos económicos de las familias que se producen por causas

estos años por la crisis económica a diferencia de la renta de garantías y de la prestación de complemento de vivienda que son derechos subjetivos

y por tanto están supeditadas a la voluntad de los gobiernos hay cuatro palabras

asignación justificación gasto y previsión si bien la gestión de las aes lleva su complejidad debido a que el gobierno vasco es quien aprueba una orden anual que emana de un decreto señora garrido

en los presupuestos de la comunidad autónoma año a año y sin embargo

y he de apuntar que no siempre se recogen todas las solicitudes ni se contestan todas las denegatorias además

informáticos el grupo socialista solicitó recientemente el documento definitivo sobre el estudio

a instancias del departamento de empleo y políticas sociales el objeto de este informe

sobre las familias vascas segundo cómo han cambiado los perfiles de las personas perceptoras de las aes

su distribución territorial y muy importante analiza en qué medida existen diferencias intermunicipales en la financiación de estas ayudas y cómo ha variado en los últimos años la aportación de los ayuntamientos sobre estos puntos voy a centrar mi exposición para llegar a mi propuesta final que lanza el grupo socialista

hay una notable reducción de la aportación de los municipios vascos a la financiación de las ayudas de emergencia social que pasaron de aportar siete coma cinco millónes de euros en el dos mil ocho

en el dos mil doce los ayuntamientos vascos aportaron un millón seiscientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y dos euros a la financiación de las aes

en el dos mil trece se produce un punto de inflexión los ayuntamientos vascos aportaron cinco coma tres millónes de euros y para este año y según lo previsto aportarán millónes de euros el doble que el año pasado esto señorías es una prueba más que evidente de que la crisis económica está castigando a las familias vascas que están surgiendo nuevas necesidades que han derivado en un incremento notable de las solicitudes de las ayudas de emergencia social registradas en los ayuntamientos

las que están paliando situaciones de pobreza y exclusión social en euskadi en los presupuestos del dos mil catorce efectivamente hay previstos veinte coma tres millónes de euros para las ayudas de emergencia social

a las preguntas que ha hecho este parlamento esa cantidad no es suficiente para cubrir el cien por ciento de las demandas en cuanto al número de personas perceptoras de las aes han pasado de treinta y siete mil quinientos ochenta en dos mil doce a veintisiete mil cuatrocientos veintitrés en dos mil trece en su mayoría mujeres entre cuarenta y cincuenta años

gastos propios del mantenimiento de la vivienda y necesidades primarias estos dos gastos suman un total del sesenta y cinco por ciento este año dos mil catorce frente al cincuenta por ciento que sumaban el año pasado

considerablemente pasando prácticamente a la mitad de solicitudes

del dos mil trece se debatió en este parlamento una proposición no de ley sobre la publicación de la orden que regula las aes

a finales del dos mil catorce si bien sí era posible ver cuál era su evolución en el primer semestre y basándonos también en el hecho

si hay mayores ingresos de los previstos inicialmente en los presupuestos una parte se destinase a incrementar la partida de las aes

los socialistas planteábamos propuestas para afrontar las necesidades emergentes

que vivimos y no fue posible el acuerdo porque ustedes

ahora sí que están reconociendo ya indicábamos que el departamento de empleo y políticas sociales estaba elaborando un estudio en profundidad para

y dejando claro que el partido socialista no pedía nada que contravenga la ley de la que emana el decreto ni que entre en colisión con la renta de garantías y la prestación

planteábamos entonces lo mismo que planteamos hoy

no puede quedar solo al arbitrio de la voluntad del gobierno

hoy los socialistas salimos de nuevo a esta tribuna planteando propuestas para afrontar las necesidades emergentes en la actual de crisis económica y partimos de un análisis exhaustivo de la demanda real de las ayudas de emergencia del porcentaje de cobertura que se ha dado

en un diagnóstico social actual y considerándolas preventivas y paliativas de situaciones sobrevenidas por la escasez de recursos económicos máxime en los momentos de crisis económica que estamos atravesando y los datos permiten evidenciar los planteamientos que los socialistas traemos a esta cámara

en la transacción que hemos firmado con eh bildu he de decir que en el cuarto punto se recoge lo que ya nosotros planteábamos en junio porque creemos que precisamente ese informe que se ha emitido por el cis así lo justifica nosotros lo que hacemos es instar al gobierno vasco que en base a los efectos y al impacto que la crisis económica está produciendo en las familias vascas y teniendo en cuenta

proceda a la modificación del decreto cuatro barra dos mil once incorporando un artículo a fin de garantizar la cobertura suficiente para

de las ayudas de emergencia social que se produzcan a futuro con carácter coyuntural y como consecuencia de situaciones de crisis económica como la actual

enmienda transaccional hemos incluido este punto y los otros tres puntos ya eran los que ya suscribimos el año anterior por lo tanto concluyo mi intervención mostrando la satisfacción por el acuerdo alcanzado y en la convicción de que se ajusta perfectamente a las necesidades

de emergencia social en un marco de crisis económica aguda que afecta de lleno a las familias vascas que menos recursos tienen

eta besteak ez tampoco podemos olvidarnos del artículo

que regula las ayudas de emergencia social porque entendemos que es muy claro respecto a la obligación que tienen los ayuntamientos de minorar la cuantía máxima

para dar cobertura por igual a la demanda de todas las personas solicitantes

y décimos que es importante este decreto muy importante por tres motivos principalmente uno

la fecha de aprobación dieciocho de enero de dos mil once gobierno socialista con

es imperativo deberá reducir cuando antes su carácter era dispositivo y tercero todo ello

y no dejar a alguna fuera porque su situación de emergencia se produzca más tarde en el curso del año es necesario detenernos en este último aspecto porque tiene a nuestro juicio el mismo derecho a solicitar estas ayudas una persona que se encuentre con una situación de emergencia en enero en julio en octubre o en diciembre siempre y cuando evidentemente cumpla los requisitos establecidos en la normativa en vigor

por lo tanto pongamos en valor la normativa actual en su totalidad porque este último artículo también forma parte de la regulación de las ayudas de emergencia social

el compromiso de euzko abertzaleak y del gobierno vasco con la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social es firme

el propio lehendakari urkullu así lo expresaba el sistema vasco de protección social la dignidad de las personas que peor lo están pasando aquellas que están en riesgo de exclusión destacó que gracias a la solidaridad de la sociedad vasca

de los umbrales de la marginación y la pobreza mantener el sistema de protección social es una prioridad

a garantizar cada mes que este apoyo llegue a todas esas familias que lo necesiten refiriéndose a las ayudas contempladas en la ley como derecho subjetivo la rgi y la pcv pese a las dificultades económicas

de quienes no creen en la solidaridad con las personas en situación de dificultad el gobierno vasco

muy importante por mantener la cobertura regulada en la ley por ello nos parecen injustas las manifestaciones realizadas por los portavoces de otros grupos tratando de presentar a un gobierno despreocupado con las necesidades básicas

sobre todo porque saben que no es cierto cuando hablan de voluntad política no es un problema de voluntad política es un problema de disponibilidad presupuestaria como lo hemos repetido hasta la saciedad este gobierno está preocupado por todas las personas por todas las personas independientemente de su procedencia

el departamento de empleo y políticas sociales consiguió incrementar la partida para las ayudas de emergencia social gracias a ahorros provenientes del propio departamento que también

este año también sea posible ampliar la partida para dar respuesta a las solicitudes así como para ampliar las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral el gobierno

y está trabajando para darles una respuesta lo más satisfactoria posible pero a día de hoy no hay disponibilidad presupuestaria por lo que no se puede ampliar la partida destinada a las ayudas de emergencia social

no podemos aprobar la solicitud de ampliación de la misma aunque insisto el gobierno está trabajando y continúa trabajando en este sentido por lo tanto

tampoco respaldaremos el punto segundo puesto que está íntimamente relacionado con el primero respecto al tercero

ya tendremos tiempo de hablar sobre este aspecto en cuanto se presente el proyecto de presupuestos esperemos a examinar las partidas y ya tendremos tiempo de solicitar el incremento de las mismas si así

no creemos que este sea el momento para ello decía el lehendakari hoy mismo

no contemplarán recortes sociales por lo tanto insisto esperemos

venimos otra vez con este debate tiene razón ojalá no tuviéramos que hacerlo utilizamos casi todos los grupos los mismos argumentos

subjetivo pero nosotros pensamos nosotras pensamos que esta es una situación coyuntural y esperamos que así sea además y que el año que viene no tengamos que volver a presentar una proposición como esta ojalá sea así ojalá se cumplan esas previsiones que ustedes dicen que

entonces seguramente habrá menos solicitudes de ayudas de emergencia social seguramente

ojalá ojalá sea así dice usted que por qué hemos metido el tercer punto sobre los presupuestos de dos mil quince que llegará el debate ya pero es que creemos que tenemos que tocar todas la puertas haber si alguna se abre porque como aquí acordamos cosas que luego no se cumplen

los ayuntamientos están obligados por decreto a aminorar no todos lo hacen es cierto

irresponsable o no desde luego a nosotros nos parece absolutamente responsable porque lo que intentan es cubrir todas las solicitudes que les llegan a la ventanilla del servicio de base todos los días y qué es lo que hacen para cubrir la partida de ayudas de emergencia social cuando no les llega tiran de sus propias partidas partidas propias

consignadas y reguladas generalmente para la lucha contra la pobreza son partidas que están creadas para atender a solicitudes que se quedan fuera de otras ayudas de las ayudas de emergencia social o de la rgi con lo cual tienen que tirar de esa partida para cubrir las aes y quién sale perdiendo

desfavorecidas y para que esto no ocurra qué es lo que hace algunos ayuntamientos incrementar esas partidas propias

lo voy a sacar yo voy a poner un ejemplo donostia en el año dos mil catorce

donostia a principio de la legislatura tenía una partida propia de lucha contra la pobreza de doscientos mil euros a día de hoy en el año dos mil catorce esa partida

han tenido que hacer ese esfuerzo de incrementar su propia partida

otras necesidades hoy podría darse la circunstancia de que alguna persona algún grupo parlamentario

podría darse esperemos que no sea así podría darse el caso también de que algún parlamentario

en algún ayuntamiento después de solicitar por escrito en base a un acuerdo plenario al gobierno vasco que aumente la partida aquí votase en contra podría darse esa circunstancia suena extraño pero esas cosas pasan

porque el martes se recogían unas declaraciones a colación de un acto al que acudió el lunes pasado y decía la solidaridad

a salvaguardar la dignidad humana no podemos estar más de acuerdo suscribimos las palabras del lehendakari ahora sí que les pedimos que pasen de los titulares

en la vida misma hay que ser un poco coherente por lo menos

sus planteamientos entonces señora sarasua no me vale aquí que usted

pero luego cuando llegamos al debate concreto de presupuestos ante una enmienda del partido popular

el partido socialista respaldó al partido nacionalista vasco y en consecuencia a este gobierno para no incrementar la partida de veinte millónes quinientos mil euros que ahora ha resultado insuficiente y que ustedes ahora

pidiendo que se dote con más dinero la partida presupuestaria eso es una clara

tenga muy acostumbrado el partido socialista pero espero que esta vez

coherentes y desde luego es una seña de identidad y en esta cuestión de forma

qué hacen pero es que el año pasado ustedes votaron que no al incremento de la

lo imposibilitaron si no hubiera salido porque el resto de grupos estaban a favor obviamente no estaba a favor el partido nacionalista vasco

yo creo que estamos ante un asunto de clara voluntad política como estamos ante un asunto de voluntad política de compromiso

la cuenta con la actividad que tenemos en este parlamento las ayudas de conciliación y este gobierno

con las políticas relacionadas con el bienestar social de la ciudadanía vasca y con las políticas sociales y se están produciendo recortes ustedes alardean de que no hacen recortes que son otras administraciones públicas las que hacen recortes

en las ayudas a las personas o a los alumnos con especiales dificultades y esa es la realidad que estamos viendo

en la que los presupuestos hay ajustes presupuestarios y también el gobierno vasco es momento de priorizar

no está priorizando como debe de priorizar y eso hace que las políticas sociales estén sufriendo claros recortes y un ejemplo hoy es el tema de las ayudas social y mire le he dicho el asunto concreto de la suficiencia financiera lo debatimos a propósito

en el dos mil ocho y fue un debate muy interesante en la ponencia y los grupos ahí presentes estaba la señora zabaleta estaba la señora

que participamos de forma muy activa para ver cómo plasmábamos esto en un texto legal y ya lo he recordado las palabras de la señora mendoza si fue ella la que decía

un artículo concreto que decía que se tenía que cubrir de manera suficiente las ayudas de emergencia social es que por eso lo hicimos porque como no se nos estaban cubriendo y los gobiernos de turno se escudaban que por cierto hasta entonces también eran los suyos

no había un artículo y no había una disposición expresa que contemplara eso pues por eso se contempló por lo tanto creo que está claro que este gobierno no tiene voluntad política y compromiso con las políticas sociales y que es un gobierno que nos

y platillo el eslogan de que está preocupado por las personas pero a la hora de la verdad desde luego no están y las personas más vulnerables y las personas que realmente lo necesitan no están en el centro de la acción política de este gobierno y mire señora

blanco

el ayuntamiento de donosti por causas obvias me imagino pero yo también voy a traer el ayuntamiento de vitoria a colación es que no solo complementa esa cantidad que le resulta insuficiente por parte del gobierno vasco es que tampoco

porque el alcalde de vitoria gasteiz lo tiene claro las ayudas para las personas que realmente lo necesitan y por lo tanto si con el dinero que le llega del gobierno vasco como no es suficiente pues no va a dejar a personas tiradas que van del ayuntamiento en este caso de vitoria gasteiz esperemos que esta vez este

mandato parlamentario porque creo que la voluntad de este parlamento una vez más en esta cuestión está muy claro eskerrik asko garrido andrea

que organizaba eapn la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social

hay que tenerlo en consideración porque desde luego tiene toda la razón señora garrido

esto es una propuesta del partido popular en el ayuntamiento de bilbao no la voy a leer porque no la quiero leer pero desde luego no piden ampliación de las aes piden otra cosa usted selecciona la pobreza ustedes

le dice que personas tienen que seguir siendo pobres y que personas pueden acceder a las ayudas por lo tanto lecciones

las justas al grupo nacionalistas vascos

pero ustedes lo que decían en el dos mil nueve y en el dos mil diez

ustedes están ahora en el gobierno les toca lo que les toca y yo creo que no deben de perder la realidad de la que estamos viviendo porque las circunstancias han cambiado y mucho tanto han cambiado que están recogidas en el informe de gestión de las aes yo he dado los datos en mi anterior intervención y desde luego

es muy importante y los hechos son los que son porque las palabras se quedan en un papel recogidas pero tienen que hacer acompasadas por lo hechos y eso es lo que nos da credibilidad en la política

los datos son los que son las aportaciones de los ayuntamientos han sido las que han sido y ahora hay un punto de inflexión muy importante en el que a día de hoy la previsión

que la del año pasado y le voy a decir que diez veces más que la del anterior con lo cual ahí señora arregi y recuerdo lo que decía aider mendoza es que lo tengo apuntado

planteaban lo que hoy precisamente han anunciado que van a votar en contra decían este acuerdo tiene un contenido que es importante pasamos de la obligación de la ley a la voluntad del gobierno porque estamos hablando de personas que están en situación muy delicada y que tienen dificultades para hacer frente a gastos calzado gafas prestamos intereses de vivienda hoy esas personas son muchas más y muchas las que se están quedando fuera porque no se están recogiendo sus demandas

pues parece que bueno no va a ser así por lo que estoy viendo en este momento quiero decir que hay casi

ni prestación por desempleo ni un subsidio y este dato es alarmante porque significa que casi el cincuenta por ciento de las personas que están en situación de paro

autónoma no cobran ningún tipo de prestación del estado señora garrido y dependen de la renta de garantía de ingresos de la prestación de complemento de vivienda

y entiendo que esto es importante y el actual gobierno vasco no se puede amparar en que las aes no son un derecho subjetivo y que tiene un carácter

es ampliable pero claro esto depende de la voluntad del gobierno por eso nosotros planteamos modificar un decreto que evidentemente ese decreto

no hay nada de malo en eso y que ahora se pueda pedir que se refleje una situación que coyunturalmente existe que está ahí y que los datos los avalan en el dos mil once

en el dos mil trece cinco coma tres y en el dos mil catorce diez millónes la situación ha cambiado considerablemente y el número de demandantes de las aes también no los que está recibiendo sino los demandantes

también y eso es muy importante y quiero recordar que ha sido el partido socialista de euskadi quien ha luchado por hacer una reforma fiscal a la que algunos partidos se negaron en la anterior legislatura y que en este momento los datos demuestran que la recaudación ha subido por encima

a permitir destinar parte de esa recaudación a temas como ha dicho usted las ayudas de la conciliación familiar y laboral y por qué no las ayudas

y también quiero recordar que hay muchos ayuntamientos que han ampliado las partidas económicas pero también voy a poner en valor los que están gobernados por los socialistas como son barakaldo

y esto es un reflejo que complementa otros muchos ayuntamientos que la mayoría están aportando por mi parte nada más y muchas gracias eskerrik asko sarasua andrea

legebiltzarburu andrea señora garrido no sabe cuánto me alegra

las podía haber hecho cuando estaba apoyando y sosteniendo al gobierno socialista y lo mismo para la señora sarasua cuando se presentó esta enmienda usted dice que nosotros hemos cambiado de postura etcétera

ya le hemos discutido sobre este tema en varias ocasiones y hemos leído las palabras de la señora zabaleta que además en ese momento era consejera por lo tanto no vamos a entrar en discusiones

pero me hace gracia que traigan las palabras y pongan en valor las palabras de la señora mendoza en un día como hoy cuando en realidad ella presentó la iniciativa no se las tuvieron en cuenta y votaron en contra y no modificaron y no ampliaron la partida como se le solicitó

el cuarto punto de la enmienda transaccional que habla sobre la modificación

cuatro barra dos mil once se lo he dicho en mi primera intervención si quieren cambiarlo cámbienlo en su totalidad porque también obliga

también obliga no si quieren cambiar el decreto cámbienlo y además le recuerdo que ese decreto

también parece que no le parece no sé si suficiente hay que ir a más